señoras y señores parlamentarios parlamentarias señor lehendakari señor consejero

y paso a defenderla también en estricta coherencia con la interpelación

la presente moción decíamos al consejero de empleo y políticas sociales que la ley de cooperativas anunciada

y nosotros la considerábamos fundamental y queremos que en ese sentido entre en dos mil quince sin falta

regulación cooperativa y nos aseguró que están trabajando y esta afirmación nosotros la queremos apuntalar

desde luego algunas de las razones que han sido provocadas por agentes externos pero queremos que la ley venga comentaba en la interpelación

la situación en un proceso de reforme legal de la regulación cooperativa y decíamos que

de cooperativas de euskadi de mil novecientos noventa y tres marcó un importante paso en nuestra tierra pero también en el conjunto de españa en lo relativo a la regulación de esta forma emblemática de economía social la ley de cooperativas de euskadi supuso un referente supuso

ejemplo jurídico que siguieron además otras comunidades autónomas donde la implantación cooperativa era relevante y era parte sustancial de su economía y

que pudimos hacer desde aquí tuve el honor de representar en aquel momento la ponencia parlamentaria en la tramitación de aquel texto legislativo bueno ahora parecía que tocaba la revisión de esta ley pero esa no llegaba el paso del tiempo

las exigencias de la unión europea los procesos que han afectado a la administración

todos las podemos conocer y desde mil novecientos noventa y tres han pasado cosas han pasado cosas que todos podemos valorar

desde luego la evolución de las empresas de economía social pero también

hay importantes referencias jurídicas hay un informe interesante

la economía social en la unión europea recientemente elaborado que también

que utiliza el último documento elaborado por el gobierno vasco para el comité económico y social europeo en relación con estas cuestiones efectivamente la conferencia permanente europea de cooperativas mutualidades asociaciones fundaciones habla de los pasos que hay que seguir dando

de las cortes generales de dos mil once el estatuto de la sociedad cooperativa europea que también fue ley de las cortes generales de dos mil once la carta dos mil diez

el informe toya dos mil nueve una resolución importante del parlamento europeo el propio dictamen a partir de los informes del consejo

distintos tipos de empresa nuestras propias elaboraciones

y los análisis que las universidades o que el propio observatorio vasco de economía social han hecho pues hacen que tengamos una serie de cuestiones sobre las que haber reflexionado

en las empresas y en estas también hay necesidades de transparencia de control interno en las cooperativas en los procesos de decisión y otras cuestiones

que la reforma era necesaria es necesaria y parecía que así también lo entendía desde luego

como también lo ha dicho el gobierno también entiende que es necesario esa reforma de la ley esa nueva ley

que pueda tener pero efectivamente abordar el tema este parlamento ha tenido a lo largo de dos mil trece y de dos mil catorce

auspiciadas por la universidad del país vasco en colaboración además con el propio parlamento y donde hemos podido hablar y hemos podido debatir hemos podido escuchar decía el otro día a la propia universidad a su instituto derecho economía social

de economía social a expertos a representantes del sector

en las comisiones a los representantes de las comisiones parlamentarias a la propia dirección de economía social del gobierno vasco y parlamentarios pues hemos podido analizar hemos podido observar interesantes reflexiones y aportaciones en relación con estas cuestiones

sí que hemos podido analizar la cuestión pero sí que hemos podido entender que la reforma es necesaria el gobierno vasco anunció vuelvo a repetir

la aprobación y la remisión del parlamento vasco de la ley de cooperativas de euskadi

cuál es el objeto de la regulación que aparte del debate parlamentario que podamos tener

que inciden pero que el gobierno que sí que detalla que la razón básica del proyecto legislativo es la refundición

bastantes además esa refundición pero por razones de sistematicidad facilidad en la identificación y utilización de una norma en vigor bastante compleja por otra parte

añadida de armonización para la interpretación coherente del cuerpo legal de aclaración en otros casos

también de la función de inspección habla de cooperativismo de vivienda habla de aspectos puntuales

también serán muchas cosas que tiene que ver con cuestiones que vienen de fuera que vienen de la unión europea las cuestiones que forman parte de la necesidades

han hecho patentes que hay que analizar seguramente cuestiones de contabilidad y procesos que forman parte del día a día del sector cooperativo

regulación independientemente de que ya lo comentábamos en la interpelación de que la fecha anunciada inicialmente para su aprobación en el consejo de gobierno y su remisión al parlamento vasco era el primer semestre del dos mil catorce

y sigue siéndolo y con la moción es seguir profundizando en las necesidades de la apuesta por la economía social por el desarrollo del sector el cooperativo y los demás que componen esta fórmula económica y empresarial

acabamos de recibir la comunicación requerida por el pleno de la cámara en marzo del dos mil trece y que podrá ser un buen marco para hablar de aspectos no solamente las cooperativas el objeto sino de la economía social en su conjunto y en ese sentido también quizá para hacer alguna reflexión en relación con el debate de la cuestión legislativa

esa comunicación que hemos recibido y que debatiremos para los próximos meses seguramente nosotros se lo hemos manifestado queremos ser constructivos queremos ayudar al gobierno en pasos de consolidación y de fortalecimiento del conjunto de la economía social en euskadi

el resto de fórmulas ahí están hablaremos de ello seguramente en un debate constructivo y en ese sentido

que esa ley ese decreto legislativo ese proyecto ley esa reforma de la ley la fórmula

que tenga pero que venga una buena ley que venga pero que venga pronto eso es lo que tratamos de hacer con nuestra moción

ahí está queremos que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a que concluya a la máxima brevedad yo creo que es bueno porque antes hablábamos también de las nuevas leyes o de las leyes que vengan y sus procesos complejos de elaboración pues bueno yo creo que en este caso ya estamos hablando de algo que tiene que estar

que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a que concluya a la máxima brevedad los trabajos de preparación del anteproyecto de ley de cooperativas de euskadi con el fin de que en dos mil quince sea remitido a la cámara para su debate y aprobación

esperemos que sea cuanto antes para que nosotros también en esta cámara cuanto antes empecemos a estudiarlo a analizarlo a enmendarlo y lo más importante a aprobar el mejor texto para la nueva regulación de las cooperativas para euskadi muchas gracias

lehendakari señorías el asunto que nos trae hoy el partido popular como ha dicho el proponente no es de control esperábamos que al menos fuera de impulso pero en fin pero nos parece que no apremia tampoco al gobierno

y entendemos que ni siquiera llega un pellizco de monja es bastante

la iniciativa estando de acuerdo con el propósito del proponente de activar al gobierno para que lo haga pero es que el retraso es el elemento fundamental de la acción de este gobierno el retraso en muchos aspectos de los que no voy a hablar porque si no se dirá que me aparto del objeto del debate

el calendario legislativo sí y no hay más que ver que las leyes aprobadas en este parlamento en su mayor parte son proposiciones de ley es decir incubadas en el seno del propio parlamento no las que ha los proyecto que ha traído el gobierno

la interpelación que le formulaba el señor barrio planteaba que la comunicación sí había venido con cierto retraso desde que se solicito y aducía a la maternidad de la directora de economía social

informe es del periodo dos mil diez dos mil doce y que queda desactualizado no se si es un embarazo muy largo o que la historia

gobierno seguidamente hablaba de la caída de fagor

los agentes que intervienen en el ámbito de las cooperativas y todo esto daba lugar a ulteriores reflexiones de las que tampoco tenemos noticia a día de hoy

por otra parte estaban también las apelaciones del señor consejero a la prudencia

lo que pasa es que no sabemos quién responderá de esas palabras en el futuro porque ciertamente

el desmantelamiento de su estructura de gobierno va a suponer en el futuro nuevas justificaciones

otras dilaciones y así el gobierno va saliendo como puede por la claraboya en cada debate y la prueba de ello es que en su interpelación

en los que solo tenemos competencia de ejecución de la regulación estatal sin embargo sin embargo le hemos preguntado por escrito y por vía oral tanto euskal herria bildu como el grupo socialista

y la respuesta que está escrita porque aquí todo se hace con soporte documental dice que esto es muy complejo de elaborar un registro sin la referencia normativa de la ley y resulta que todas las comunidades autónomas en territorio común tienen su registro entonces no entendemos muy bien cuál es el planteamiento del gobierno en esta materia sí solo tenemos

que no se pueden hacer y luego resulta que por otra parte es muy complicado en fin y por no hablar de otro propósito del departamento que también planteo en las respuestas a su interpelación señor barrio que plantea que la mesa tripartita va a introducir al ámbito cooperativo ese jardín por supuesto me hace atisbar una montaña

para también argumentar dilaciones que habrá en el futuro nosotros a diferencia de usted señor barrio al que le vemos muy benévolo en esta cuestión y le aseguro que yo hago un elogio de la templanza

desquiciado como el que vivimos pero nosotros no estamos aquí para templar gaitas creemos que hay que activar al gobierno hay que ponerle deberes concretos porque usted en su moción señor barrio

aspecto al que ya se comprometió el propio consejero en su interpelación es decir por lo tanto le insta a hacer algo que el gobierno parece haber asumido

por eso nosotros en la transacción en el primer punto en la transacción que hemos alcanzado con eh bildu planteamos que un año de retraso después es suficiente

y vamos a poner horizontes temporales al trabajo primer trimestre del dos mil quince y en segundo lugar que reelabore el calendario legislativo además en

la propia presentación del calendario en el que se establecía que este instrumento de planificación debe concebirse como un documento dinámico que se debe ir rediseñando

de las eventuales variaciones que se produzcan en función de las nuevas necesidades pues bien atendido el hecho de que debe de ser un instrumento dinámico

ese calendario legislativo ya no se puede cumplir al menos en las previsiones iníciales reelaboren el calendario legislativo y hagan uno que sea acorde

con los plazos que el gobierno estime pertinentes aquellos que considere que puede cumplir ahí no le ponemos deberes pero reelaboren el calendario legislativo porque el actual el que se presentó ya

de ninguna manera de manera que pasemos del calendario juliano al gregoriano y vayamos ya directamente a un calendario que sea perfectamente factible de poder ejecutar

más y más retrasos y para que no nos encontremos con el clásico vuelva usted mañana

nos plantea un dilema filosófico y es el gobierno

el modo menos útil para la sociedad vasca de gobernar o por el contrario es que no es capaz de remar al ritmo que exigen los tiempos reconozco que yo no soy capaz de resolver la disyuntiva pero lo que sí

los socialistas vamos a seguir remando en la misma calle poniendo proa a la inacción y a la contemplación por eso hemos alcanzado esta transacción

arratsalde on guztioi el programa legislativo de la décimo legislatura

la producción normativa del gobierno y es muestra de su compromiso firme en avanzar hacia una gestión más eficaz ajustada y moderna de los recursos públicos

actualizando adaptando y perfeccionando en la medida que las necesidades sociales los exijan por circunstancias sobrevenidas

a los compromisos adquiridos por el lehendakari iñigo urkullu en sus comparecencias ante el parlamento vasco en sus sesiones del dos y ocho de mayo de dos mil trece

en las que se comprometió en elaborar y remitir al parlamento este documento

al incumplimiento sistemático de los plazos que se fijó el propio gobierno llegamos a pensar que uno este gobierno carece de prioridades a la hora de legislar improvisa dos no es capaz de cumplir con lo que el mismo gobierno definía como una gestión eficaz ajustada y moderna

esto es lo que le prometía a la ciudadanía vasca lo que es un incumplimiento flagrante de la palabra dada desde un gobierno

tres si el gobierno no es capaz de gestionar ni bien ni mal lo que dice que va a hacer cómo podemos llegar a pensar el resto de ciudadanos que puede llegar a resolver otras necesidades

con cierta celeridad o incluso con garantías de poder cumplir con dichas demandas cuatro el lehendakari y su gobierno no se toman en serio a este parlamento ya que no cumple con lo que nos presenta y ni tan siquiera es el propio lehendakari el que nos da explicaciones al respecto por el incumplimiento de sus objetivos de gobierno por lo menos

iré centrando el debate sobre la enmienda que se nos presentaba por parte del grupo popular el texto

que es que no fija fecha alguna más allá de la propia voluntad del gobierno y claro teniendo en cuenta que el gobierno no cumple ni poniendo él mismo las fechas imaginémonos qué podría llegar a pasar

por esa misma razón presentamos una enmienda realista ya que no pedimos que cumpla ni lo que dijo que iba a cumplir sino que pedimos que pueda llegar a cumplirlo dándole al gobierno un nuevo plazo de tres meses extra más los cálculos no son que el gobierno tiene tres meses para traer el anteproyecto sino que a los por lo menos seis meses que lleva de retraso que sumarían por lo menos otros seis meses desde que se fijó el propio gobierno la fecha de presentación le sumaríamos otros tres meses más es decir

quince meses para realizar su trabajo consideramos que es ya más que suficiente talde sozialistak aurkeztu zuen zuzenketa bide onetik doala uste dugu

heldu gara akordio batera desde eh bildu creemos que este debate no debe coartarse más por varias razones por un lado

dos veces se ha debatido al respecto las dos veces yo mismo dije y vuelvo a repetir que ese tema debía ser tratado de manera directa en la nueva ley de cooperativas

el anteproyecto ahora sin embargo estamos a varios desde el incumplimiento nuestro compromiso de no entrar a ese debate porque era interesado ya que no pretendía solucionar el problema de los afectados y afectadas sino que pretendía mantener un debate que había superado esta cámara

los cuales ya estaban condenando a las entidades financieras que engañaron a los ahorradores para comprar las aportaciones subordinadas repito ese compromiso se circunscribía únicamente a la fecha inicial ese plazo ha concluido hacemos un nuevo ofrecimiento esta vez al gobierno damos unos meses más para cumplir del nuevo año dos mil quince en enero del año que viene prepararé la pnl que pida la derogación de ese artículo el gobierno tendrá tres meses para que yo pueda retirarla

no podemos aceptar que una ley permita ese tipo de productos financieros

de la ley de cooperativas la otra de las razones por la que creemos que este debate debe realizarse ya

teniendo en cuenta tanto las cuestiones positivas como las negativas del cooperativismo vasco que nos han traído hasta aquí

podremos desde el poder legislativo hacer una puesta estratégica que permita avanzar este modelo de empresa hacia una nueva época de necesidades

local y cercano a las personas para ello necesitamos hablar

etcétera de estas y otras cosas deberíamos hablar y queremos hablar y cuanto antes creemos que mejor beraz epe berriak bete eta ekarri legebiltzarrera

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd zurea da hitza únicamente para decir que votaremos a favor de la propuesta original no hemos planteado

correcta la iniciativa con lo cual más allá de que

y una enmienda transaccional que puede ser también razonable nosotros nos mantenemos en la idea original de votar la propuesta del señor barrio

agradecer al señor maneiro y al señor urkola el apoyo de sus grupos a la iniciativa

señor itxaso y al señor lópez de munain comparto

los argumentos que han manifestado en relación con cuestiones que yo no he querido traer para fijarme en lo importante

la iniciativa porque les ha permitido criticar sacudir un poco al gobierno y además anuncias iniciativas parlamentarias que están muy bien que el efecto de esas iniciativas parlamentarias se concreten dentro de la materialización del proyecto de ley que nos traiga el gobierno

es posible yo quiero ser constructivo en este tema y soy crítico

porque yo he sido el primero trayendo la iniciativa anuncié el retraso y lo critiqué

y yo pongo en mi iniciativa como usted ha visto que yo digo que

es un concepto jurídico indeterminado así como concepto jurídico o como concepto temporal pero la

ya sabe el gobierno en una fase de retrasos lo que debe de ser

está para eso para que el gobierno la traiga yo

en el primer semestre del año que viene esa iniciativa tiene que estar aquí para que entre para que se califique

si puede ser en el primer semestre mejor

le puedo asegurar de la experiencia de la ley de mil novecientos noventa y tres del proyecto de ley de mil novecientos noventa y tres es un estudio parlamentario bastante complejo es una ley que tiene su complejidad aspectos jurídicos societarios

económicos de reforma de algunas de las cuestiones y de valoración de algunas de las cuestiones que no han funcionado bien y además hay que hablar con el sector que también es heterogéneo y es variopinto en relación

en que yo no sé cuál será el totum revolutum del resto de los proyectos de ley o iniciativas del gobierno que efectivamente hay que criticar los retrasos y efectivamente ha formado parte de otros debates parlamentarios

queremos y mi grupo quiere que el gobierno a la máxima brevedad posible presente un proyecto ley importante

en estos aspectos de regulación de la economía social lo hemos sido en el pasado en españa ahora europa

la serie de informes de leyes que nos marcan determinadas necesidades de regulación queremos superar los recelos y las reticencias de parte del sector cooperativo no los entendemos han podido ser causa de algunos de los retrasos en la actuación del gobierno vasco

bastante avanzado nos consta que tiene que tener bastante avanzado el estudio de este proyecto de ley y entendemos que esa máxima brevedad no nos cabe duda que

entiendo que en pocos meses muchas gracias eskerrik asko barrio jauna itxaso jauna zurea da hitza

recoge la interpelación las palabras del señor consejero que dice y confiamos que tal y como he manifestado el año que viene sin ninguna duda este texto entrará en la cámara qué dice la moción

nosotros no tenemos una particular digamos predilección por

sinceramente para nosotros sería más interesante estar debatiendo ahora sobre si la responsabilidad de los socios cooperativos es universal e ilimitada o no

objeto de debate pero no podemos hacerlo tenemos que hacer un debate digamos de transición y lógicamente y usted lo ha dicho en un tono quizás mucho más benévolo pero efectivamente hay elementos para recodarle al gobierno que los retrasos

empiezan a ser moneda de curso corriente la brevedad la brevedad creo que es una unidad de tiempo para el gobierno

si han dicho dos mil quince será en dos mil quince y probablemente más al final que al principio que la elaboración de esa ley

devenido en los últimos tiempos razón de más razón de más para que ese debate

era de traer y

transacción y la variación que hay entre la enmienda inicial que hacemos y la transacción alcanzada claro la enmienda inicial lo que plantea es fijar una posición

ese calendario no se puede cumplir y entendemos entendemos que el gobierno al margen de que no salga esta transacción adelante debiera en coherencia con sus propios postulados

a las circunstancias y a las fechas que quedan de aquí a fin de legislatura y plantear plantear un escenario más realista porque el que se dibujó en su momento ya se ve

y por lo tanto esa debiera de ser una de las tareas que el gobierno debiera acometer rediseñar ese calendario

obsta en modo alguno para que el gobierno se dé cera y traiga cuanto antes ese proyecto de ley pues no

porque nosotros desde luego el día de mañana invocaremos más el compromiso del señor consejero que el acuerdo parlamentario porque lamentablemente el acuerdo parlamentario

no sé cómo decirlo señor barrio pero es demasiado edulcorado

no nos parece que esa moción consecuencia de interpelación realmente aporte algo distinto algo nuevo

en fin encender al gobierno sus luces para ponerse en movimiento porque realmente de esa forma con ese tipo de oposición se va a sentir muy cómodo

nosotros no disfrutamos sacando a relucir este tipo de reproches nos gustaría más estar debatiendo sobre lo que es el objeto lo que es lo nuclear realmente el mundo de las cooperativas economía social

cómo solventarlos si ese problema de imputación de pérdidas cómo se resuelve en fin esos son los temas que nos interesa y tendríamos que estar a ello y no a recordarle al gobierno
que no ha traído los deberes nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna

una fecha límite a este gobierno uno porque nos están coartando el verdadero

o de las cuestiones que pueden estar afectando a las cooperativas hoy en día

que se nos parece que se nos está coartando porque parece que las propias necesidades o aquellas demandas que pueden estar teniendo las propias cooperativas son las que están marcando el calendario legislativo de este gobierno

o que podamos darlo hoy en esta cámara ya que el portavoz del partido nacionalista vasco ha venido a defender esas necesidades y esa

generar problemas a las cooperativas pero el problema no es ese el problema es que de lo que deberíamos estar hablando porque esto esta iniciativa realmente de lo que trata

un retraso generalizado en todo lo que ha sido o está siendo el programa legislativo se nos presentaron veintinueve iniciativas de las cuales catorce de ellas perdón diecinueve de ellas están más o menos

y se han cumplido cinco es decir si quitásemos las otras diez que estaban planteadas para el dos mil quince

que se habían traído con unas fechas concretas habían presentado en ese calendario legislativo no se está cumpliendo eso es un problema

que creemos que había que haber traído por lo menos a esta cámara porque más allá de lo que pueda ser las propias necesidades del sector

no es el sector o no es el resto de los grupos el que trae esa necesidad legislativa creo entender sino que fue el propio gobierno el que lo introduce dentro de la agenda política

a nivel estratégico y sobre todo desde el poder legislativo cuáles son las herramientas que se pueden poner para el funcionamiento de las cooperativas entendemos que ese debate debe de abrirse lo que no entendemos ahora tampoco es que quienes vayan a marcar los tiempos que haya puesto el gobierno vayan a ser las propias cooperativas

ha dicho el señor barrio están poniendo un impedimento real sino lo que están poniendo son unas cuestiones encima de la mesa para que las atendamos cuando llevemos a cabo ese debate ese debate habrá que hacerlo señor aburto no hay que hacer ese debate no hay que cumplir

que no es verdad pues usted tendrá que explicarlo no usted tendrá que explicarlo bien y usted tendrá que explicarlo entonces si la razón del que no lo traigan es esa misma pero más allá de lo que pueda ser verdad o no lo que es verdad es que este gobierno está incumpliendo su propio calendario legislativo lo está incumpliendo en el setenta por ciento existe una inactividad por parte de este gobierno

posiblemente legislativa de toda la que podía ser la acción de gobierno y ustedes cuando estaba el anterior gobierno vasco presidido por la persona que ya no está aquí

que llegó al poder gracias a la ilegalización de un partido político hablaban claramente de cuál era la propia inacción del gobierno y tanto el señor

el señor ortuzar refiriéndose al incumplimiento del calendario legislativo que llevaba a cabo el partido socialista de euskadi y afirmó que es el gobierno del renuncio porque anuncia cosas y pocos meses después renuncia a llevarlas a cabo creo que se deberían empezar a aplicar el cuento porque son

cómo se puede pedir un escenario realista una adecuación del calendario

cuando se da una explicación de porque una ley no llega pues lo que decía belarri batetik sartu eta bestetik atera no nos damos cuenta no queremos atender

solicitado no es que el gobierno no quiera traer aquí esa ley sino que el propio sector solicitó que ante los asuntos que estaban surgiendo

deberían de decirle a ellos deberían decirles a ellos que no están de acuerdo con que se haya retrasado el que

deberían de decirle a las universidades que han estado trabajando durante este tiempo también que han andado lentos que tenían que traer la ley antes lo que no se puede es ahora y

el procedimiento todos los informes que requiere una ley para saber o no saber si se pueden traer en tres meses señor barrio yo no he dicho que

pero cuando se pide un calendario realista lo que no se puede

una proposición que se califica por sí sola porque si lo que se plantea es algo

ya está por si sola calificada beraz

que hacía mención el representante de bildu irían relacionadas con estos retrasos que en su día también se hablaban de que

se retrasaban que algunas iban a ser delimitadas y hoy que hemos aprobado una ley casualmente hoy cuando se aprueba una ley municipal y cuando hoy a la mañana se aprueba una ley

lo que diesen las estadísticas en cuanto a plazos en cuanto a presentación de lo que anteriores gobiernos han hecho

y señor itxaso únicamente se puede descabezar lo que tiene cabeza lo que no tiene cabeza no

sí gracias presidenta buenas tardes desde que hace medio año

denunciara el fraude masivo que representa que el gobierno vasco haya estado financiando de forma irregular a un determinado grupo de comunicación afín

han ocurrido varias cosas que únicamente recordaré uno se ha constatado una amplísima mayoría parlamentaria que ha censurado ese trato de favor noticias y ha obligado al gobierno vasco a cambiar ciertas prácticas dos lo que en un primer momento fue un número limitado de informaciones ha ido aumentando y se ha constatado que al menos durante el año dos mil trece hubo un masivo apoyo de todos los departamentos del gobierno

del grupo grupo noticias tres el tema está en los tribunales y será la justicia la que finalmente decida qué

existen en nuestra opinión miembros del gobierno vasco podrían llegar a ser imputados esto en todo caso se verá en los próximos meses y cuatro

a cambiar sus propios criterios y se ha comprometido a modificar su política de patrocinios pero hoy no estamos para volver a insistir

irregular del gobierno en este apoyo descarado e ilegal a un grupo de comunicación afín al gobierno que ya hemos debatido varias veces y seguramente seguiremos tratando

la denuncia del intento de engaño tergiversación y manipulación de este parlamento llevada a cabo por el portavoz del gobierno vasco el señor josu erkoreka cuando un representante político miente voluntariamente y conscientemente debe irse cuanto antes

nos tenemos que remontar al pleno de control del día veintisiete de junio justo cuando este tema de la compra de espacios publicitarios de forma irregular acababa de ser denunciado

relacionadas con las irregularidades cometidas por el gobierno en la contratación de publicidad institucional como punto previo debemos aclarar que casualidad ese día el gobierno entregó en el parlamento la memoria de publicidad y comunicación institucional no una semana o un día antes sino ese mismo día con lo que el portavoz contaba con la ventaja de tener unos datos

desconocíamos y como punto previo digamos también que es el señor erkoreka como portavoz el responsable del gobierno para los asuntos de comunicación

al manipular sin rubor los datos incluidos en esa memoria manipuló y mintió a sabiendas de que los datos que estaban dando no eran exactos que estaba tergiversando y manipulando realidad cuando hemos tenido tiempo y hemos podido analizar la citada memoria nos hemos encontrado con múltiples falsedades que en ese momento al desconocer los datos incluidos en la misma no pudieron ser rebatidas dijo el consejero textualmente según la transcripción de la sesión y en referencia al reparto de la publicidad que el gobierno está siendo escrupuloso en el reparto de los espacios

la difusión entre los medios de comunicación más adelante dijo que se daba una correspondencia

y el reparto de publicidad en medios por parte de este gobierno

legalidad escrupulosamente respetada principio de objetividad e imparcialidad en el reparto de la publicidad en los medios absolutamente incontestable por parte del gobierno pues le vamos a contestar de forma absoluta para demostrar su manipulación

sus argumentos y demostrar que mintió y manipuló y lo vamos a hacer con sus propias fuentes según los datos oficiales de cies acumulados de dos mil trece en prensa escrita el correo tenía cuatrocientos sesenta y cinco mil lectores el diario vasco doscientos sesenta y dos mil deia ciento cinco mil gara laurogeita bost mila el país sesenta y siete mil

diario de noticias de gipuzkoa veintinueve mil y diario de noticias de álava

si agrupamos por grupos empresariales de comunicación tal y como hace el gobierno en sus datos de la memoria el grupo vocento tendría setecientos veintisiete mil lectores y el grupo noticias conseguiría

el grupo vocento tendría cuatro coma cincuenta y siete lectores desde luego esta correspondencia no se produjo en el reparto de la publicidad institucional ya que según los datos de la memoria al grupo vocento se le adjudicaron contratos por valor de novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos nueve euros

euros tal vez la forma más gráfica de ver que no se ha sido ni puntual ni escrupuloso ni objetivo ni imparcial sea viendo lo que

obtuvo dos coma setenta y cinco euros por cada lector el grupo vocento consiguió uno coma tres euros por lector el país obtuvo uno coma tres euros por lector gara se quedó en uno coma dos euros por lector y berria llegó a uno euro por lector es decir el grupo de comunicación más afín al gobierno

en lectores se puede calificar este reparto como escrupuloso lo consideran ustedes este reparto como

si observamos la política gubernamental en las radios los datos resultan todavía mucho más escandalosos

para dos mil trece así nos encontramos con que la ser tendría doscientos treinta mil oyentes radio euskadi doscientos diecisiete mil

cadena cuarenta ciento diecisiete mil euskadi irratia noventa y seis mil

onda cero setenta y tres mil y en octava posición onda vasca

excluimos radio nacional que no contrata publicidad pero que en número de lectores también supera a onda vasca y en el reparto económico nos encontramos lo siguiente radios del grupo e i te be trescientos treinta mil quinientos diez euros grupo prisa trescientos mil onda vasca doscientos veintiuno mil ciento cuarenta y cinco y a mucha distancia onda cero con

la conclusión es que efectivamente se ha hecho un reparto bastante escrupuloso entre las radios pero con una excepción de nuevo con la más afín al gobierno

corresponder por audiencia las radios del grupo prisa recibieron cero coma ochenta y seis

las radios de la radio televisión pública vasca menos cero coma setenta y dos euros por oyente onda cero y grupo nervión que tienen unos pocos oyentes más que onda vasca recibió cero coma ochenta y dos euros por oyente

respectivamente y finalmente onda vasca obtuvo una financiación del gobierno de casi cuatro euros

recordemos que esta última es la octava radio en cuanto a audiencia en la

y la que mayor financiación recibe del gobierno de forma proporcional a sus niveles de audiencia con gran diferencia

recibir cuatro veces más de lo que le correspondería por niveles de audiencia señor erkoreka es esto un reparto escrupuloso imparcial

nuestros datos son incontestables no hay reparto escrupuloso ni mucho menos objetivo y por supuesto tampoco imparcial lo que sí hay es un reparto muy parcial para defender a los amigos del gobierno por otro lado

pues bien siguiendo con el análisis de su propia documentación hay cuarenta y cinco patrocinios y acciones divulgativas referidas a la actividad propia de los medios de comunicación y de ellos veintiséis casi el sesenta por ciento se los adjudicaron al grupo noticias por comparar

seis y estos son los lideres en radio y prensa escrita respectivamente se pueden poner algunos ejemplos de la proporcionalidad la equidad y la justicia en el trato de la que presumió en el pleno de control el señor erkoreka únicamente pondré algunos ejemplos aunque podrían ponerse muchos más o algunos más

de administración pública y justicia onda vasca recibe cuñas

mientras que onda cero recibe cinco mil trescientos setenta y seis y nervión mil quinientos once euros ambos le superan en audiencia

se insertan anuncios en todos los periódicos y en una sola radio

dos campañas puertas abiertas en parques tecnológicos y euskal txerri en las que se inserta publicidad en la radio pública y en una sola radio privada de nuevo solo en onda vasca actuaciones informativas de empleo y políticas sociales deia veinticinco mil noticias de álava dieciséis mil el correo

diario vasco berria o el país nada cero euros acciones informativas de osalan grupo noticias

el correo cero diario vasco cero gara el país cero el mundo cero berria

se han justificado varias veces incluso el propio lehendakari lo ha hecho diciendo que los patrocinios son acciones que proponen los propios medios de comunicación y que el gobierno si las considera adecuadas las acepta y por supuesto las paga este es un argumento falaz

en el mismo grupo es una forma tramposa de saltarse la ley de publicidad institucional

a quien interesa al gobierno con cantidades además arbitrarias porque nunca se ajustan a las tarifas estándares de publicidad sino que se rige por otras acordadas entre

y en este caso además hemos llegado al extremo del engaño porque por definición cuando se paga por patrocinar algo es para que se vea la marca para que se sepa quién está detrás de la acción es decir para obtener un beneficio invisibilidad y prestigio el gobierno paga por no aparecer como se ve con todas las cifras anteriores el portavoz del gobierno tergiversó los datos mintió y engañó a la cámara lo que es gravísimo en una democracia parlamentaria intentó manipular y tergiversar la verdad que el gobierno ha estado financiando de forma irregular a un determinado grupo de comunicación afín a su partido político y a su ideología como fue

lo que significa escrupuloso la exactitud en la averiguación o el cumplimiento de un cargo o encargo

sobre si algo es o no cierto si es bueno o malo

y la conclusión es de nuevo clara no hubo exactitud y creo que en el gobierno no tuvieron ninguna duda de conciencia para favorecer al grupo de comunicación más afín independientemente de que los datos no les dieran la razón hubo manipulación es decir hubo una intervención con medios arteros

todo lo contrario se propició la desigualdad y se aplicaron criterios subjetivos para favorecer al grupo noticias es decir el señor erkoreka

consciente y voluntariamente no es que se le despistara algún dato o que cometiera un error sino que lo hizo voluntariamente

que había ocultado hasta ese día al parlamento y lo utilizó de forma artera y torticera y mintió al negar que había dado trato de favor a un grupo de comunicación amigo creo que los datos son evidentes

nosotros presentamos esta iniciativa con el objetivo de que el parlamento vasco repruebe al portavoz de este gobierno por mentir en esta cámara gracias

esaten duzu zuk intentar justificar el uso fraudulento e irregular de dinero público zuk

el uso fraudulento e irregular de dinero público hori egiten duzu zuk politikatik

señores consejeros hay veces que resulta complicado afrontar el debate de una proposición no de ley a veces por su contenido

maneiro el mérito en la presentación de esta proposición no de ley y el trabajo realizado yo creo que es una proposición no de ley y esto que no es habitual lo quiero decir que precisamente por el contenido por cómo está trabajada

también me resulta algo complicado porque tengo que reconocerle al señor erkoreka un respeto político muy sólido

de personas concretas a mí me gusta mucho más debatir sobre políticas concretas pero en este caso concreto

señor egibar usted es hábil pero no tanto

salir a esta tribuna y defender cosas que son difícilmente defendibles

pero no tanto y cuando a uno le pillan si me permiten esta expresión

amenazante acusador a quien ha pillado lo que hay que responder por lo menos es con un poco de humildad y yo creo que no valen en este debate los juegos de manos ni

ni se votó no sé dónde compareció no sé quién no estamos hablando de eso señor egibar no estamos hablando de eso

en detrimento de otros en función de la línea editorial de unos y otros está mal claro que está mal eso ya lo hemos debatido claro que camuflar publicidad institucional

y utilizar ese camuflaje como publicidad de parte o partidista está mal claro que está mal pero eso ya lo hemos debatido

es de que un miembro de este gobierno que además es su portavoz compareció en esta cámara y no nos dijo la verdad eso es de lo que estamos hablando eso es lo que justifica la presentación de esta proposición no de ley todo lo demás sobre lo que usted ha intentado o lo que usted ha puesto sobre la mesa y cómo ha intentado desviar el debate

analizando un comportamiento político manifestado en esta cámara en esta tribuna y las mentirijillas en política no existen

o no se dice la verdad o hay dolo o hay error pero se dice la verdad o no

no nos dijo la verdad no nos dijo la verdad y lo supimos luego se ha sabido porque ha habido un trabajo parlamentario insisto y no me canso de reconocerlo un trabajo parlamentario exhaustivo que lo ha identificado y de esto es lo que estamos hablando hoy el señor erkoreka se va librar hoy

o es censurable no decir la verdad también el señor erkoreka es muy hábil pero no tanto

pero no tanto como para desviar la atención en una materia como esta y el gobierno vasco a permitir que utilice una cita que al señor erkoreka le sonará

le hablo desde el interés por la higiene pública como la mujer del cesar el gobierno no solo ha de ser honesto

me parece que en esta ocasión la imagen del gobierno desde el punto de vista de la honestidad ha dejado mucho que desear esto se lo dijo el señor erkoreka en el congreso de los diputados en un debate

pues yo creo que hoy este gobierno con esta

ha salido tocado también salió tocado con la mala utilización con la mala praxis de la publicidad partidista y partidaria y salió

también hoy el partido nacionalista vasco con esa actitud prepotente cuando le cazan también sale tocado yo creo que todos podemos aceptar errores

que rocen eso que no existe en política es la mentirijilla y es la mentira si luego hay un poco de humildad

y el señor erkoreka nos dijo que el gobierno había sido imparcial nos dijo que había sido escrupuloso y que había sido transparente

características del gobierno son ciertas porque se ha sabido y porque se ha identificado entonces

si no tenemos claro que cuando el dinero público no se utiliza de una manera transparente es censurable

y en humildad en el ejercicio de la política mal vamos por eso nosotros hoy a pesar de lo que he dicho al principio le vamos a sacar no una tarjeta roja pero sí una amarilla al señor erkoreka

una tarjeta amarilla y vamos a votar a favor de la proposición no de ley

los hechos denunciados damos por hecho que el gobierno al menos va a tener

pero estaremos vigilantes todos ahora bien no damos por hecho que ningún político no mienta y eso también vamos a seguir siendo muy escrupulosos en el control y aquí en este parlamento

el portavoz del gobierno nos engañó y eso merece una censura muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

muchas novelas y películas de género negro la trama argumental se basa en una persona honorable

y que pretendiendo ocultarlo por temor a sus consecuencias va encadenando error

hasta llegar al crimen salvando las distancias

a lo que le ha sucedido al portavoz del gobierno señor erkoreka con el asunto de la publicidad institucional encubierta contratada con los medios del grupo noticias

es cogido en un renuncio con varios contratos de publicidad suscritos con los medios de un grupo de comunicación muy vinculado al partido nacionalista vasco

el grupo socialista el que puso el foco en este asunto con una pregunta escrita presentada en diciembre del dos mil trece concretamente sobre unos contratos realizados

abierta al conjunto de medios y lo que resulta más reprobable en abierta colisión con lo que establece la ley de publicidad institucional de dos mil diez y del código ético

propaganda y autobombo no publicidad y segundo porque se intenta colar como información sin advertir a los lectores y escuchantes de esos medios de que lo que ha leído o escuchado ha sido pagado

una hipótesis plausible el gobierno del pnv incurrió en estas prácticas en el dos mil trece

entre otras cosas porque probablemente era la forma de funcionar habitual antes de que el pnv

en el dos mil nueve y se aprobará la ley de publicidad institucional

y vuelvo a la trama el gobierno ante la contundencia de las pruebas en su contra tuvo la oportunidad clarísima señor erkoreka de reconocer el error pedir disculpas y prometer que evitaría en el futuro esas prácticas pero no lo hizo sin embargo

se lanzó a una loca carrera de auto justificación que no hizo sino empeorar las cosas y aquí se significó el señor erkoreka como portavoz y responsable de comunicación del gobierno al menos esa es la función que usted debiera desempeñar en una memorable sesión de control el veintisiete de junio pasado el consejero portavoz no solo quiso explicar lo inexplicable

había sido ejemplar que no había habido mala utilización de recursos públicos que no se compró información en ningún caso que no se ocultó al público

que todo fue en resumen una inocente operación

pero no acabó ahí hasta se permitió el lujo de afirmar que lejos de haber beneficiado al grupo de comunicación mencionado el gobierno casi se había quedado corto

textuales de la publicidad institucional y el consejero portavoz se permitió lanzar ese farol utilizando de forma ventajista la memoria de publicidad

que por cierto no se había entregado en ese momento al parlamento algo parecido a lo que hizo el señor aburto la semana pasada entregando la encuesta sobre la pobreza cuando el último grupo de la oposición ya había intervenido en este parlamento parece que es una costumbre de este gobierno

según le conviene en cualquier caso en esa memoria de la que usted presumió y nos dio una determinada serie de datos que ha explicitado el señor maneiro los datos parece evidente que concluyen exactamente lo contrario de lo que usted dice es decir que el grupo noticias recibió un trato privilegiado y desproporcionado

teniendo en cuenta su audiencia y no solo eso sino que cuando habló usted de esta memoria hizo dos cosas que me parecieron muy graves

consecuencias primero lanzar un aviso al resto de medios de que cuidadito con lo que décimos y cómo tratamos esta noticia no sea que el grifo institucional del dinero se pueda acortar

sobre la oposición eso también estuvo en su intervención

no logro convencernos de la correcta actuación del gobierno sino que causó un serio esguince a la verdad de tanto que retorció los argumentos y la propia

y si yo fuera usted señor consejero no tendría ganas de sonreír en su escaño si yo estuviera sentado ahí haciendo lo que usted hizo oyendo lo que va a oír todavía en este parlamento estaría simplemente abochornado y avergonzado

permítame el adjetivo yo creo que dejó usted también muy tocado el propio código ético

cito textualmente a ser capaz de transmitir veracidad credibilidad y no recurrir al engaño o a la distracción o encubrimiento de los problemas

es decir exactamente lo contrario de lo que usted hizo aquí el veintisiete de junio pasado y fíjese si fue descarada su defensa de lo indefendible

tuvo que enmendarle la plana unos días más tarde en la diputación permanente

que lo que su consejero portavoz no había hecho es decir que no era tan intachable la actuación que a él no le satisfacía y que se habían cometido errores y que se comprometía a corregirlos en el futuro y no es la primera vez que el lehendakari le ha tenido que corregir a usted por excesos verbales o por intentar falsear la realidad y por lo tanto creo que es algo que a mí me preocuparía si fuera el portavoz del gobierno

en la que se pide la reprobación por el parlamento de la conducta del señor erkoreka

aquí no hemos venido a hablar de aquella actuación eso lo discutimos en la diputación permanente que se celebró en julio aquella en la que compareció el lehendakari

y por cierto no fue ninguna puesta en escena para afear al lehendakari no sé qué o para hacer alguna pantomima política

hizo comparecer a patxi lópez en este parlamento para hablar de unas palabras sobre el contrato social con la ciudadanía

en cualquier caso creo que llegando a este punto y hablando de lo que estamos hablando el hecho de que su propio jefe tuviera que sacarle a usted señor erkoreka de la zanja en la que se metió creo que ya es bastante correctivo

portavoz del gobierno yo lo que espero es que este portavoz el señor erkoreka haya aprendido al menos de este episodio para que en el futuro sea más prudente

otro miembro de este gobierno el consejero de hacienda intervino también sobre este punto y lo hizo con otro talante

y pidiendo disculpas y reconociendo errores y probablemente le digo otra cosa el lehendakari de este gobierno probablemente no hubieran tenido ni que comparecer en la comisión permanente de este parlamento si usted no hubiera hecho aquí el papelón que usted hizo

de control por eso nosotros consideramos conveniente en este caso darle una perspectiva de futuro

de su reprobación porque no nos preocupa tanto bajarle los humos al consejero cuanto que el gobierno rectifique lo que hizo mal y le vamos a dar mañana

contestando a una pregunta del grupo parlamentario respecto a si ha empezado o no a realizar alguna gestión para recuperar el dinero que ilícitamente se entrego al grupo noticias porque no nos vale a una contestación que ha hecho a este parlamentario a una pregunta

porque está bajo investigación judicial correcto eso es cierto pero también es cierto que este gobierno se dotó de un código ético

que está para cumplirlo y por lo tanto tendría la obligación de corregir un desmán que como tal se ha reconocido en la propia enmienda del partido nacionalista vasco que por cierto es toda una reprobación encubierta hacía usted de que aquello no se hizo como se debía por lo tanto espero

acabe con esta votación continué mañana en el pleno de control y el lehendakari sea capaz esta vez sí definitivamente de cerrar una historia que nunca debió producirse poniendo en marcha todo las medidas necesarias para recuperar

gracias al señor sémper por anuncias el voto favorable a esta iniciativa yo

todos los grupos voten a favor de esta iniciativa que pretende reprobar al señor erkoreka por mentir en sede parlamentaria no podemos admitir que

institucionales y mucho menos el portavoz del gobierno venga a la cámara a manipular los datos y no solo a manipularlos sino explícitamente a mentir como usted hizo en aquella sesión yo comprendo que el grupo nacionalista vascos haya tenido que echar mano de un peso pesado como el señor egibar para hacer frente a este debate pero

ustedes no tienen salida está perfectamente demostrado que el señor erkoreka mintió en aquella ocasión y lo hizo

ni siquiera lo importante hoy es lo que ha venido realizando el gobierno en relación a la publicidad institucional no es eso lo importante estamos hablando hoy de la mentira en política pensamos que la mentira consciente es admisible en política o pensamos que no este es el asunto una cosa es equivocarse una cosa es cometer errores y todos los cometemos una cosa es desviar la atención o disimular

parlamentario señor erkoreka pero otra cosa muy distinta es mentir descaradamente y encima no reconocerlo

es que el señor erkoreka mintió en esta cámara y tienen que decir que la mentira es absolutamente

de compromisos de cara al futuro en relación a la publicidad institucional no es el debate ese no es el asunto le repito el señor erkoreka habló de reparto en relación a la publicidad institucional absolutamente incontestable escrupuloso objetivo e imparcial cuando él perfectamente que eso era radicalmente falso este es el asunto él sabía que estaba mintiendo porque conocía los datos unos datos por cierto que todavía nosotros

sabía que mentía y nosotros no estamos dispuestos a aceptar a que se mienta de esa manera dice el señor egibar que no hay mala fe cómo que no hay mala fe claro que hay mala fe

por lo menos de mala fe primero cuando se decide sobre financiar descaradamente a los amigos a un medio de comunicación afín voluntariamente no ha habido ningún error hubo una decisión política de sobrefinanciar claramente al grupo noticias por parte de este gobierno y segundo capítulo de mala fe ya digo cuando el señor

a mentir a esta cámara les voy a leer unas cuantas noticias que han salido en los medios de comunicación en los últimos meses dimite la estrella del gobierno de merkel por plagiar el ministro de defensa era más popular que la canciller

como consecuencia del escándalo por haber plagiado su tesis doctoral hace unos años la renuncia es un golpe considerable para el gobierno de merkel que había respaldado a su ministro contra las críticas hasta el último momento

era el más probable delfín de la líder democristiana

lo tachó de mentiroso y pidió su cabeza estas cosas se hacen en algunos países de nuestro entorno más avanzados en fin y más transparentes

sobre una multa de tráfico hace diez años para no perder los puntos que le quedaban en el carné de conducir

y no él quien iba al volante se descubrió que mintió y tuvo que irse a su casa por mentir no porque le pusieran una multa por mentir este es el asunto estamos hablando por lo tanto de la mentira dimite el primer ministro del estado de nueva gales del sur por mentir sobre un regalo que recibió

que un empresario le regalara una botella de vino valorada

no dimitió por recibir la botella que valía más de dos mil euros

por decir que no había recibido esa botella de vino es decir otra vez por mentir así se actúa por lo tanto en países de nuestro entorno

a mentir descaradamente a sabiendas con mala intención para engañar a los parlamentarios para engañar al parlamento y para engañar a las ciudadanía nosotros consideramos no puede seguir en su puesto o que al menos debe recibir la reprobación contundente de este parlamento creo que los datos son claros y creo que los argumentos también

decir que el señor erkoreka ha vuelto a mentir no tengo tiempo de esto pero efectivamente acabamos de recibir una respuesta parlamentaria a una nueva pregunta en relación a una cuestión relacionada con la publicidad institucional no tengo tiempo para explicarlo

a mentir en este caso al grupo upyd en relación a unos datos que se le pedía y usted señor erkoreka lo sabe perfectamente han sido pillados nos parece absolutamente impresentable que ustedes utilicen el recurso de la mentira para confundir a la sociedad para engañar a la ciudadanía y para

señor pastor el siete de julio es que pudimos presenciar físicamente cuando ante la solicitud de comparecencia cursada por ustedes la iniciativa

y la doble iniciativa las dos pnl que había para tomar decisiones

arrancara a dar sus explicaciones ustedes ya cerraban la enmienda sí señor físicamente se cerró allí se firmó y he constatado la situación

se decidió al inicio de aquella diputación permanente que las dos iniciativas se iban a discutir evidentemente conjuntamente y de votar se tendría que votar la del señor

y así ustedes suscribieron la enmienda de totalidad que no suscribió eh bildu pero que sí votó a favor no había incompatibilidad ética al parecer estética eso fue lo que sucedió pero cuando el lehendakari arranca a dar sus explicaciones

no pudimos ni exhibir nuestra posición es más yo intenté con este texto y uno similar un acercamiento a las posiciones

la verdad ya había sido rebelada y es verdad que los acontecimientos se sucedieron como todos conocemos pero ha habido muchas iniciativas a este respecto yo hablaba del retardo en la reacción porque si tan grave es la situación por qué no incluyó usted el primer pleno

por qué no lo incluyó porque estaba usted esperando a la oportunidad

su propaganda bien pues está usted en su derecho hemos presentado una enmienda de totalidad que además

es coherente con la comparecencia del lehendakari el siete de julio se advierten lagunas

yo le dije al lehendakari lehendakari eskerrik asko por no ser perfecto porque la perfección es atributo de los dioses

no hemos andado bien del todo en este tema y vamos a corregir y el compromiso ético el de la transparencia etcétera es que cuando se habla de erkoreka y se intentan calificar primero las loas

si la columna vertebral de la actuación del gobierno está en la transparencia y ustedes dicen bueno esa memoria a la que accedió él

qué es que no sabe leer o qué porque será no sé si buen brillante o brillante parlamentario hábil político

ni mentiroso no habrá satisfecho las tesis de algunos los porcentajes que se exhiben en una comparecencia

dos mil once diez coma seis millónes dos mil doce

que es una línea de trabajo y una política y dentro de esas cantidades se trabaja con criterios de transparencia y proporcionalidad y el que aparezca la carátula o el subrayado

programa o información patrocinada en un determinado medio de comunicación nos lleva a todo esto nos trae a todo esto habrá que corregir habrá que depurar pero es que el ciudadano no advierte

necesita de la ayuda de este parlamento para distinguir lo que es publicidad e información

pues eso es un error es un error el que no haya reclamado el gobierno en su caso en el contrato no se haya incluido esa cláusula evidentemente es un error

que dice lo siguiente el parlamento vasco rechaza las prácticas que supongan la difusión de campañas institucionales de publicidad que no se identifiquen como tales y que no incluyan la mención expresa de la administración o entidad promotora o contratante

instamos al gobierno a no contratar actuaciones de patrocinio o publirreportajes que puedan inducir

o a confundir publicidad con información vale será teoría de publicidad está en la ley pero hay que cumplir

lo que estamos diciendo es que la conducta y la actuación del gobierno se debe guiar sobre estos principios

se han admitido no irregularidades sino disfunciones
evidentemente se han producido se ha reconocido eskerrik asko egibar jauna

nada he reconocido en nombre del grupo parlamentario los errores cometidos

este gobierno desde el siete de julio desde antes cuando conoce el tema corrige las situaciones

y marca las pautas de trabajo a futuro eskerrik asko sémper jauna zurea da hitza

después de su primera intervención y habida cuenta de la actitud tradicional de la izquierda abertzale cuando se trata del partido nacionalista vasco que ustedes se arrugan